no quiero comenzar esta intervención sin denunciar el auténtico escándalo vivido por esta institución el parlamento vasco ya que desde antes de navidad hasta hoy

el parlamento nos cuesta a todos los vascos treinta y cinco millónes de euros al año

hagamos cuentas de las sencillas y además las entenderá todo el mundo han pasado cincuenta y seis días desde aquel dieciocho de diciembre en el que presentaron las cuentas

casi dos meses de parlamento infrautilizado de trabajo en vano por parte de todos los grupos de la oposición para finalmente aprobar unas cuentas prácticamente

les daré para despertar sus conciencias algunos datos que muestran los servicios o ventajas que todos hemos perdido en estos días de rodillo y postureo democrático

con esa cantidad se podrían haber pagado ciento treinta y cuatro mil pruebas pcr

labores de rastreo cuidado de pacientes refuerzo de plantas etcétera

este es el escándalo de la política vasca una situación que solo tiene un responsable y es el gobierno estirando el chicle de los presupuestos y su pantomima democrática para simplemente consolidar el mensaje de apariencia de diálogo

en el gobierno ustedes saben de la corrupción de la democracia en demagogia su degradación natural según aristóteles espero que sean conscientes de que con su actitud

en eso en convertir nuestra democracia en pura demagogia vivimos en el tiempo de las apariencias qué duda cabe pero quizá conviene tener algo en cuenta a la moral

no son de recibo cuando tenemos a miles de personas en la ruina a otros tantos sostenidos mediante un esfuerzo mayúsculo de la administración que no puede durar para siempre y muchos muriendo en una terrible pandemia que ustedes no saben cómo atajar en cualquier caso volviendo al tema que nos reúne hoy aquí lo cierto es que una vez aprobado el presupuesto general de la comunidad autónoma vasca

pues como saben no hay posibilidad de mover el dinero sino de gestionarlo dentro de cada sección sin poder cambiar las cantidades ya prefijadas en este contexto

enmiendas parciales cuyo objetivo básico es poner un pequeño componente de cordura y en otros casos denunciar la cantidad de posibilidades existentes

son como he dicho doscientos diecisiete enmiendas que suponen mover unos doscientos dieciséis millónes de euros dentro del propio presupuesto

programas de nueva creación y proyectos ambiciosos que hoy se pierden a favor de la nada o mejor dicho de que todo siga igual como si nada

como si la vida no nos hubiera cambiado y no nos hubiese demostrado que juntos somos más fuertes que no existe autodeterminación

sino que los vascos dependemos de los riojanos navarros murcianos extremeños del resto de españoles para ser que todos somos uno

más fuertes seremos como sociedad como vascos y como españoles voy a limitarme a resumir muy someramente algunos de los proyectos principales sobre los que se han construido nuestras enmiendas

y no son medidas de vox no son las medidas que vox defiende en sentido estricto sino que nacen de la necesidad de adaptarse al marco hemos hecho varias enmiendas con un mismo fin

y que siguen quedándose en segundo lugar son varios los focos en donde centramos nuestros esfuerzos y sobre todo cabe destacar la especialización de delitos y la investigación sin olvidar cuestiones como el equipamiento el comercio local lleva mucho tiempo desangrándose frente a dos rivales de naturaleza distinta por un lado

que juegan con varias ventajas desde capacidad de compra posicionamiento en las ciudades

horarios más amplios todos recordamos al menos los de cierta edad la llegada de este formato de comercio a las ciudades y el duro golpe que supuso para el pequeño comercio sin embargo ese enemigo no iba a ser el principal ya que por otro lado con la aparición

la cuestión se ha complicado aún más ahora deben enfrentarse a un gigante que no tiene ningún problema en practicar el dumping

y además declarando fuera del país ruina doble por un lado para los empresarios y por otro lado para la sociedad nosotros más allá del asunto fiscal creemos que se pueden ganar varias partidas por la mano a este tipo de plataformas en especial aprovechando otras empresas que ya existen en nuestras ciudades convirtiendo

inmediata y por supuesto con un catálogo mucho más amplio hemos hecho una enmienda en este sentido y estaríamos encantados de que alguien del gobierno la recoja para potenciarla

también hemos previsto ayudas a la hostelería tenemos que tomarnos este asunto en serio proponemos generar fondos específicos que vayan en este sentido

ayer ya lo vimos hay dos momentos resistir la pandemia y relanzar el vuelo una vez esta vaya retrocediendo creemos que ambas cuestiones van de la mano por eso invertir en innovación para hacer más eficiente nuestra hostelería nos ayudará a ser algo más fuertes tras esta difícil y dura situación

somos el epicentro de la hispanidad o al menos uno de los centros de esta sin embargo ustedes lo ocultan como quien barre y guarda la porquería debajo de la alfombra

y hundidas la covid ha terminado de acabar con la natalidad qué hacer potenciar la conciliación laboral

las familias son lo primero debemos protegerlas y además debemos potenciarlas este es el resumen de nuestras propuestas iniciativas que buscan sumar

salir de la caverna para ver cómo el sol de un gran país nos ha hecho grande a todos gracias eskerrik asko martínez andrea

muchas gracias señora presidenta miembros de la mesa señor lehendakari miembros del gobierno vasco señorías en nuestro sistema el parlamento como saben tiene tres funciones aprobar las leyes controlar al gobierno

de hecho la aprobación del presupuesto es la más antigua de las tareas de los parlamentos como bien saben y la aprobación del presupuesto tiene un poquito de las dos anteriores el presupuesto es una ley por una parte

al menos en teoría en la historia del constitucionalismo el sistema parlamentario se acaba consolidando cuando el ejecutivo necesita de la autorización del parlamento para crear nuevos impuestos nuevas tasas y para aprobar el gasto que quiere

después de toda una larga evolución llegamos a la situación actual donde los presupuestos que se aprueban en los modernos parlamentos incluye una previsión de ingresos por una parte una previsión también de gastos y una serie de modificaciones legislativas que son necesarias para implementar este presupuesto las modificaciones legislativas tradicionalmente se incluían en una ley paralela que era conocida como la ley de acompañamiento últimamente ya se están aprobando de manera

los presupuestos suponen la concreción a la realidad de lo que son los ideales los programas políticos del gobierno y de los grupos en este caso que lo sustentan establece las medidas específicas como saben que un gobierno

los presupuestos nunca deben ser nunca deben ser la concreción de las filias y las fobias que puedan tener

pueden ser unos presupuestos que hagan oídos sordos a los retos que tiene la sociedad ante sí los presupuestos para el año dos mil veintiuno

luchar contra la covid diecinueve y recuperar la actividad económica y por tanto también el empleo ese es

ante todos nosotros señorías el propio gobierno y también el parlamento y todas las instituciones públicas en cambio los presupuestos que ha presentado

son presupuestos continuistas son presupuestos que incrementan la deuda para pagar gasto corriente no contemplan ninguna reforma de importancia

no les va a dejar gestionar demasiado introducen diversas cláusulas clausulas la que permite la reasignación de partidas posteriormente huyendo

parlamentario yo no digo que no tenga que haber cláusulas de reasignación de gasto en un momento determinado cuando se produce un nuevo incremento de los ingresos pero lo que debe haber o lo que nunca puede dejar de haber es control parlamentario a este tipo de cuestiones lo contrario es falsear el presupuesto y lo contrario es falsear el procedimiento parlamentario llevamos meses

para confeccionar unos presupuestos que sean acordes con los retos que tenemos en este momento en su lugar la coalición

elaboraron como digo unos presupuestos continuistas que hacen como que aquí no pasa nada luego a la oposición para pedirnos que los apoyemos sin más hombre yo creo

con toda la experiencia acumulada que tenemos y que usted tiene muchísimo más que yo

entonces el señor azpiazu fue llamando a los distintos grupos de oposición dándoles

además luego han intentado que toda la oposición no solamente nosotros parezcamos ser los culpables de no llegar a un acuerdo

apoye los presupuestos del gobierno por si fuera poco en la comparecencia de la comisión

para presentar el proyecto pues el señor azpiazu dijo claramente

no iban a aceptar ningún tipo de enmienda que desvirtuara el proyecto hombre yo creo si me permite la reflexión que desde que tiene mayoría absoluta se están comportando ya si cabe con mayor soberbia política mayor soberbia no solamente en la sociedad que se proyecta en los medios en las instituciones que gobiernan y últimamente además se está proyectando también hacia los jueces

cada vez que les han quitado la razón y esta situación ya la verdad es que roza el acoso y esto no puede ser

hemiciclo en este parlamento y por tanto van a ganar todas las votaciones esta historia

van a ganar todas las votaciones y todas las propuestas que vaya a presentar hoy la oposición en este último trámite van a salir derrotadas por los números

que es importantísimo por lo demás los grupos que apoyan al gobierno cambien de opinión y acepten algunas de las propuestas que les hemos planteado no solo nuestro grupo sino otros grupos que componen el hemiciclo de hecho estoy casi seguro

intentarán darnos lecciones a los grupos de la oposición y acabarán recordándonos como han hecho recientemente en otros debates no me estoy inventando nada

y que por tanto no necesitan de ningún apoyo extraordinario este debate ya lo hemos vivido en diversas comisiones incluyendo la comisión de economía hacienda y presupuestos que tengo el honor de presidir y en la que solamente se han aprobado

una que era el cambio propuesta por los grupos del gobierno que era el cambio de nombre de una partida que no tenía ningún tipo de repercusión a nivel económico y otro

al tema del sáhara mire a pesar de esta situación en nuestro grupo nos hemos tomado muy en serio el trámite presupuestario el trámite parlamentario de los presupuestos

además que es que estos presupuestos son los más importantes que vamos a aprobar en esta cámara en décadas porque van a definir van a definir lo que va a ser el futuro sobre todo de la sociedad y el futuro de las siguientes generaciones

hemos trabajado a destajo con el único objetivo de que a través de los presupuestos se pueda ayudar a las familias a los autónomos a los emprendedores a las clases medias y trabajadoras para que todas puedan tener y mejorar sus condiciones de vida porque ciertamente las circunstancias actuales cada vez más gente lo está pasando realmente mal por eso es un momento siguiendo el trámite parlamentario insisto una enmienda a la totalidad la enmienda a la totalidad no es más que una petición al gobierno para que retire el proyecto que ha presentado lo reelabore y vuelva a presentar otro proyecto de presupuestos seguimos el trámite parlamentario porque evidentemente estas propuestas fueron todas tumbadas por la mayoría que gobierna y que se ve reflejada en este hemiciclo a lo que no hay nada que objetar desde el punto de vista parlamentario democrático seguimos el trámite nosotros parlamentario

de la sociedad en estos momentos todas fueron rechazadas con los votos de estos dos grupos al siguiente trámite que es el de las enmiendas parciales en ese momento cuando todos los grupos presentamos las enmiendas parciales nosotros también recibimos el presupuesto con mucho interés y además lo analizamos y trabajamos muchísimo trabajamos a destajo

con las partidas presupuestarias de presupuestos y de proyectos anteriores hicimos las correspondientes preguntas al gobierno y hemos presentado ochocientos cuarenta enmiendas ochocientos cuarenta enmiendas porque nos lo tomamos en serio ochocientos cuarenta enmiendas parciales lástima

nos jugamos mucho durante la próxima década y estos tienen que ser unos presupuestos diseñados para la recuperación de la economía y del empleo si no nos movemos si no cambiamos esto la situación cada vez será peor no tendremos otra oportunidad como esta por eso nosotros defendemos que sí que era el momento de abandonar trincheras y de escuchar las propuestas vinieran

en lugar de presentar un paquete cerrado e inamovible

se dijo aquí en trámite de comisión que no se aceptaría ninguna enmienda que lo pudiera desvirtuar no hay nada ilegítimo en esto porque el gobierno tiene perfecto derecho además cuenta con la mayoría de presentar el presupuesto que estime conveniente pero hombre luego ya echarle la culpa la oposición de que no nos adherimos

es conveniente decirlo aquí públicamente en el hemiciclo

no solo nosotros sino el resto de grupos yo me pregunto

mil y pico en total pero nuestro grupo ochocientos no era buena ninguna de las ochocientos ninguna de las ochocientos era salvable no es bueno por ejemplo incrementar la ayuda

dirá no a la escuela concertada sí le hemos incrementado ya lo que pasa es que no se le incrementa la partida destinada a los gastos de estructura que lleva congelara muchísimos años

no es bueno por ejemplo apostar por los emprendedores no es bueno por ejemplo apoyar de verdad a la hostelería

no es bueno por ejemplo apostar por la digitalización plena de la sociedad y de la propia administración

y las zonas más despobladas de nuestra tierra no es bueno por ejemplo mejorar la formación y los materiales

no es bueno por ejemplo reducir los altos cargos y dedicar este dinero a luchar contra

no es bueno por ejemplo reducir el ingente gasto que supone la televisión pública prácticamente más cara que existe e invertir esto

la vida familiar y profesional y no es bueno acaso no es bueno finalmente aumentar la inversión también en osakidetza para permitir sobretodo una pronta vacunación de la población porque

pues en fin que quede para la comisión los presupuestos que presenta la coalición nacionalistas vascos socialistas vascos son si me permiten la licencia son un poco como el día de la marmota todos los años

todos los años nos encontramos con las mismas partidas o muy parecidas con pequeñitos cambios con pequeños cambios muchas de ellas

o se ejecuta muy por debajo de lo presupuestado que se lo digan además a los grupos que en su momento pactaron o llegaron a un acuerdo presupuestario que luego las partidas además

distintos del gobierno de la oposición se quedan sin ejecutar o prácticamente o se ejecutan en menor medida no solo el año pasado me podrán decir hombre es que el año pasado señor gordillo es que usted también el año pasado fue un año particularmente excepcional no nos puede pedir que hayamos ejecutado el presupuesto bueno pero es que prácticamente se ejecutó como se suele ejecutar y esto es marca de la casa

es que siempre se ejecuta el presupuesto más o menos hasta el veinte por ciento se queda siempre un remanente del veinte por ciento en todas las partidas hombre yo creo que el presupuesto tiene que ser un presupuesto que se ajuste a la realidad y por tanto hay que ejecutarlo íntegramente si no oiga reduzcan la partida pero eso de dejar unos remanentes sin ejecutar para luego empezar ahí

nosotros entendemos que hay inercias muy difíciles de revertir y que es mucho más cómodo coger el presupuesto del año anterior hacer unas pequeñas modificaciones y sacar

los que interese en cada momento este gobierno parece que acaba de empezar parece que acaba de empezar pero es que es un gobierno que esencialmente lleva ya más de ocho años

y es un gobierno que ya da síntomas de agotamiento lo vemos en la gestión de la pandemia los varapalos que les de la justicia la falta de criterio para depurar responsabilidades políticas

es necesario un cambio de enfoque y de contenido en los presupuestos

darse cuenta de que ha cambiado la situación y de que la realidad nos ha pasado a todos por encima la pandemia nos ha colocado a todos en nuestro lugar y nos ha recordado qué es lo importante y sobre todo nos ha recordado estamos aquí todos para servir a la ciudadanía no podemos seguir todos los años con estas mismas partidas presupuestarias y el inmenso gasto corriente que tenemos insisto gasto corriente

en este ejercicio se va a financiar con cargo a la deuda está baja la deuda señor gordillo ya

porque como suba medio punto la deuda veremos a ver en qué queda esto estos son los presupuestos que nos han llevado a un callejón sin salida después de un nefasto dos mil veinte todo lo que ha pasado en el año dos mil veinte evidentemente señor consejero somos serios aquí usted me conoce no le voy a echar la culpa a la covid hombre solo faltaba pero hombre es verdad que con los presupuestos que tenemos difícilmente

prácticamente veintidós mil afiliados menos en la seguridad social y subiendo todo esto por cierto sin contar los erte

y un treinta por ciento menos de contratos firmados lo peor como siempre para el comercio y la hostelería la hostelería casi ocho mil afiliados menos más de un tercio del total y

pero también hay que mirarlo egoístamente son los futuros contribuyentes los que van a pagar el sistema social sobre el que se basa nuestro bienestar los jóvenes como digo se ha producido un incremento del treinta y seis por ciento en el número de parados por ponerlo fácil y ya lo hemos dicho aquí en esta cámara y ya se sabe dos mil veinte ha supuesto la pérdida de todo el empleo generado en dos mil dieciocho

nosotros creemos que se puede hacer mucho mejor euskadi se está quedando atrás en muchos ámbitos y lo sabemos ustedes lo saben los indicadores económicos propios y ajenos

la acción del gobierno la acción de un gobierno y sin buenos cimientos

ustedes lo cierto es que no están acostumbrados a gobernar están acostumbrados a administrar que es otra cosa una cosa es gobernar y otra cosa es administrar están acostumbrados a administrar

en un bucle sin fin hombre esto tampoco tiene mucha complicación repetir las mismas

administrar y este momento no es tiempo de administradores señorías es tiempo de gobernantes de adoptar unos presupuestos que sean ambiciosos

se nos dirá que son los presupuestos más altos luego lo comentaremos en el turno de réplica que son los presupuestos digo con mayor incremento que más

presupuestaria reciente de nuestra comunidad de euskadi se nos dirá también que son los presupuestos sociales hombre es que el estado social lo financian las comunidades autónomas a nada que haya un pequeño incremento pues claro ya se puede decir

es otra arrastramos unas inercias desde hace años que no se han querido evitar por comodidad por comodidad

el tancredismo político han preferido la gestión cómoda a sabiendas de que había indicadores que mostraban la degradación de la economía y del empleo en euskadi la pandemia

está siendo un duro golpe esta pandemia ha supuesto en todos los sentidos personal sentimental en general de estado de ánimo de la población y económico

de esta magnitud y esta tendría que ser la oportunidad para reevaluar prioridades cortar lo superfluo y racionalizar la administración desgraciadamente no ha sido así todos sabemos que hoy dentro de unas horas tres cuatro horas el proyecto de presupuestos del gobierno será aprobado y habremos perdido la oportunidad de cambiar las cosas

mano tendida la del grupo que represento no va a acabar hoy ni va a acabar aquí vienen años duros los efectos de la pandemia nos van a acompañar mucho tiempo más tiempo del que a todos nos gustaría hoy termina la tramitación de los presupuestos del año dos mil veintiuno

ojalá ojalá que en mejor situación y ojalá que ya por fin notemos los efectos de la vacuna o de las vacunas y eso permita ir recuperando poco a poco

pero la pandemia y sus consecuencias económicas están muy lejos de estar completamente olvidadas para entonces por eso

en todo lo que implique salvar vidas salvar empleos y reactivar la economía pero de verdad pero de verdad nosotros mantenemos sinceramente la mano tendida esperamos que el año que viene sí que podamos tener una colaboración real desde nuestras diferencias

a los que nos vamos a enfrentar la próxima década tal y como están los indicadores económicos no es descartable que a lo largo de este año tengamos otras comparecencias similares a esta

y volverá a salir otra vez este debate y volverá a salir otra vez esta situación de que no podemos estar permanentemente cubriendo gasto ordinario

por eso señorías hoy pedimos a la cámara que apoyen nuestras enmiendas pedimos señorías que apoyen a los emprendedores que se apoya la hostelería pedimos señorías que apoyen a la educación concertada y a las familias y pedimos señorías que se lleven a cabo las reformas necesarias

y para eso señorías tendrán nuestra mano y por eso señorías nosotros seguiremos trabajando muchas gracias eskerrik asko gordillo jauna

voy a explicarles brevemente en estos cinco minutos de los que dispongo las principales o tres principales argumentos que desde ezker anitza izquierda unida creemos destacar de las razones por las que nuestra coalición

va a rechazar hoy los presupuestos con su voto negativo en primer lugar porque pensamos que ante una crisis coyuntural

estos presupuestos no aprovechan la capacidad que tiene el gobierno para disponer de los recursos necesarios para combatir el impacto de una crisis

pensamos que es una renuncia que va a tener consecuencias sobre los sectores populares y las capas más vulnerables de la sociedad que son quienes más necesitan de la utilidad de las políticas de los servicios públicos y en definitiva de los presupuestos públicos el gobierno tenía capacidad

necesarios adicionales para respaldar los sectores económicos que están sufriendo para combatir las pérdidas de puestos de trabajo

en especial desde luego sanidad y educación pero también para cubrir desde lo público una necesidad social que ya no se puede seguir relegando al ámbito de lo privado como son los cuidados sino que la rueda de la economía no podría girar y que siguen recayendo

y en el ámbito privado fundamentalmente en segundo lugar porque creemos que el gobierno habla todos los años del peso que tienen en los presupuestos la sanidad la educación

social pero pensamos que es un ejercicio de propaganda si no se explica el modelo que sustenta los diferentes repartos por ámbitos de actuación en los presupuestos cómo se utiliza ese dinero en esos ámbitos

hace un momento que los presupuestos son la concreción

sostienen la educación privada más subvencionada de todo el estado y de toda europa mientras escuchamos a escuelas públicas que tienen que andar pidiendo cubrimientos de patios para que no se mojen los chavales o que han tenido que ver la estafa

de los comedores escolares que han costado millónes de euros tanto a las arcas públicas como a las familias estos presupuestos suponen una sanidad pública

que llevan más de diez años sin renovarse con servicios esenciales privatizados como en el ámbito de las ambulancias o las emergencias por no hablar de las derivaciones en intervenciones y por supuesto de multitud de servicios como el mantenimiento la limpieza la lavandería

un modelo que supone beneficio a costa de lo público para empresas de servicios cada vez además menos especializadas que supone precariedad laboral y que supone una degradación paulatina de la sanidad pública y unos presupuestos que en materia de protección social siguen manteniendo recortes

a los más golpeados del sistema a quienes mayor protección necesitan

en tercer lugar pensamos que son unos presupuestos que siguen negando la posibilidad de la más que necesaria reforma fiscal esto para nuestro grupo es especialmente sangrante no tanto por la necesidad de recaudación

del partido nacionalista vasco acordado con el partido socialista de euskadi pero también con el partido popular las diferencias entre las rentas del capital y las rentas de las y los trabajadores no han hecho más que aumentar esto para nosotros era

encima la crisis no debería llevarnos a posponer ese debate como afirma el gobierno al contrario lo hace más necesario que antes un modelo

los presupuestos con el modelo de gasto e inversión pública que se practica no cumplen su papel de garantes de la igualdad en las condiciones de vida material de la sociedad ambas cosas

todos tenemos que remar en la misma dirección como en una trainera pero en nuestra opinión este modelo en su conjunto más que a una trainera se parece a una galera romana
unos reman otros marcan el ritmo y los menos disfrutan de la brisa eskerrik asko hernández jauna

en el que los objetivos de política pública de pleno empleo la consolidación de derechos la ampliación de los mismos la mejora continua de los servicios públicos son

angular sobre la que bascula la política económica son los objetivos de déficit

que tenemos por delante en lugar de hacerlo justamente

por tanto y a pesar del enorme esfuerzo que han hecho todos los grupos de la oposición y en particular el nuestro también no habrá cambios no habrá cambios porque más allá

intención de modificar ni un ápice un presupuesto que es insuficiente y en algún extremo incluso remendón

para contestar a nuestras preguntas relativas a la ejecución del presupuesto anterior

para evaluar y plantear las preguntas a las y los consejeros y otro fin de semana para decidir si aceptaba la oferta del ejecutivo

se lo dije en otra ocasión al señor lehendakari y hoy lo repetiría y es que se confunde demasiadas ocasiones la negociación

y el acuerdo con cheque en blanco beraz aldaketarik ez da egongo ez delako

tampoco encontramos un gasto público discrecional que permita vislumbrar

en el futuro ni procesos que permitan revertir décadas de desregulaciones y de privatizaciones qué es lo que se ha puesto sobre la mesa en el plano macroeconómico como se suele decir as usual desde elkarrekin podemos izquierda unida creemos que

los fondos europeos los fondos europeos en el plano de las inversiones estratégicas unos fondos que claro que no se piensan decidir aquí tampoco que es precisamente la casa de la soberanía vasca sino

y por otra parte en el estado en esto que hace referencia a las prestaciones sociales y a las redes que puedan llegar para amortiguar

a la que estamos abocados son tan conscientes como nosotros de que las previsiones de crecimiento que presentaron para el dos mil veintiuno eran excesivamente optimistas ya hace unos meses y a día de hoy son simplemente falsas

de estímulo fiscal puro es nimio y por qué por qué nos preguntamos por qué y solo encontramos razones ideológicas razones de doctrina

que la actual crisis creemos que ya habría enterrado de una vez por todas

una intervención tan tibia ante lo que es ya la mayor crisis socioeconómica de nuestra historia reciente por tanto insistimos

sartuko y por qúe es lo que preguntamos también por qué guardar recursos en un cajón de sastre en la cuenta de diversos departamentos si hacen falta ahora aún no hemos recibido respuesta

de este proceso de dos meses simplemente apelaciones

ni una política de publificación de residencias ni un plan de empleo garantizado que refuerce los servicios públicos y emplee a paradas y parados de larga duración tampoco se revertirán los recortes en la rgi ni se plantea la evaluación

de un sistema de servicios sociales que está también en la uci por qué no se tiene por ejemplo la valentía para realizar la inversión necesaria

de la cartera de servicios sociales por qué seguimos sin entender que la protección social es un derecho y por qué negamos el derecho de cada vez más personas a un medio de vida digno

y a pesar de nuestros esfuerzos la verdad es que no ha habido forma de arrancar compromisos en este sentido lo dije

como pasó ya en dos mil ocho a veces resulta complicado dimensionar el tamaño del reto que tenemos por delante los presupuestos de dos mil veintiuno

shock que ha padecido nuestra economía en su historia reciente

que es primero y ante todo sociosanitario pero que ha repercutido de forma también abrupta en el sistema productivo mundial y que ha dislocado maltrecho mundo del trabajo los últimos golpes están siendo de carácter anímico incluso y pronto los brotes

probablemente de salud mental la ciudadanía vasca

vamos a una década de precarización de la vida de debilitamiento de los lazos comunitarios

y por tanto de merma de los servicios públicos de salud que evidentemente han intensificado los efectos tanto sanitarios como económicos de esta crisis pero no solo osakidetza ha sufrido el dogma del déficit cero

los servicios sociales la justicia la educación todos han sido tensionados como nunca lo habían sido y requieren de un esfuerzo extraordinario sabemos también que el tejido comercial y hostelero se encuentra al límite de sus posibilidades mientras que los grandes centros comerciales o los centros logísticos de empresas

por su nefasta política laboral están haciendo el agosto el capital internacional es el que puso de moda ese sórdido lema de que no hay crisis sino oportunidad y están aprovechando la tesitura para hacer lo que

brusca descapitalizando empresas y plantas productivas que aun en nuestro territorio son rentables simplemente porque que pueden tener más margen de beneficio en el futuro

la crisis de cuidados de la que nos han alertado los diferentes agentes sociales y especialmente el movimiento feminista

el debilitamiento de las estructuras de redistribución de la riqueza y los servicios públicos se conjuga lo décimos a menudo también con la feminización del trabajo en el hogar

la situación en muchos hogares y sectores es tan insoportable como lo es en la salud primaria y requiere de una intervención decidida y de carácter estructural una intervención que requiere la creación de un sistema vasco público

de cuidados a veces parece que les hace gracia que hablemos

es que creemos que precisamente el modelo que llevan aplicando estos cuarenta años se ha demostrado que es frágil e inestable el virus

de este modelo y como decía la situación ya para muchas personas es demasiado insoportable

en esta idea que la recuperación se debe liderar siempre desde lo público no podemos delegar la responsabilidad de la recuperación

o al capital extranjero esta fórmula ya ha sido usada y ha sido utilizada y nos ha dejado una economía caótica

desigualdad lo público requiere más que nunca de inversión y solo el sector público puede liderar una recuperación económica

digno no podemos permitir que suceda lo mismo que sucedió y esto pasa por poner en marcha una batería de políticas públicas

duintasunez necesitamos de un cambio de paradigma en la política de los cuidados

de toda su vida y además que lo haga generando empleo no precarizado todas somos codependientes

en mayor o menor medida necesitamos ser cuidadas en diferentes etapas de nuestra vida y para ello hemos hecho una serie de propuestas concretas como son el iniciar un camino hacia la publificación de las residencias

rechazaron la posibilidad de creación de una ponencia eso ya fue antes

y pensar en los cuidados que siguen siendo dispensados de forma gratuita y en las que podíamos comenzar por articular una política de corresponsabilidad que priorice el enfoque comunitario que genere red

que cuide a su vez a las redes que los y las vecinas nos demostraron como las más eficaces para dar respuestas rápidas en tiempos de pandemia

también fue rechazado propusimos regularizar los servicios domiciliarios

más equipamientos públicos y ayudas pero todo ha sido rechazado hemos insistido en que los cuidados son el principal sostén de la vida

y que resulta imprescindible blindarlos desde la responsabilidad pública creando un sistema público comunitario y seguimos así porque a pesar de que se diga lo contrario

en un modelo de privatización y de precariedad que tiene fundamentalmente además rostro de mujer

sobre nosotras dobles y triples jornadas de trabajo lo

que el impacto de la covid nos va a devolver a índices de desigualdad semejantes a los experimentados durante los peores años de la crisis anterior

inéditos y a través de este presupuesto lo que quieren es responder a este reto con un fondo covid extraordinario que es temporal y escaso

real de la cartera de servicios sociales servicios a los que cualquier persona que conviva en nuestro país tiene derecho como lo tiene también a la educación

pero estamos condicionando la actuación de las instituciones a los casos extremos y planteando una atención cada vez más insuficiente

por eso también planteamos medidas que incidan en la brecha digital que excluye que niega el acceso

y al derecho en general este era y es tiempo de garantizar que los derechos a la inclusión social y a los ingresos mínimos son independientes entre sí

por eso planteamos doblar el fondo de ayudas de emergencia social la creación de servicios de coordinación interinstitucionales que avancen en la respuesta integral del sinhogarismo

este era y es el momento de plantear políticas que sean un apoyo real para todos los modelos familiares

en nuestra sociedad este era el momento de haber aprendido alguna que otra elección del colapso sanitario vivido y sentar las bases necesarias para evitar el colapso al que están abocados los servicios sociales y las trabajadoras de los cuidados tenemos la obligación moral

y de revertir los procesos de privatización y la lógica gerencial que ustedes han impuesto a toda la comunidad sanitaria a la que han aplaudido pero con la boca pequeña puesto que se suceden unas

las huelgas en el sector sociosanitario vasco al que parecen hacer oídos sordos

han sido tumbadas es imprescindible es urgente aumentar el presupuesto en salud y avanzar

de una buena vez en la equiparación de la partida destinada para la sanidad pública

de la unión europea no podemos permitirnos tampoco dedicar menos del veinticinco por ciento del presupuesto de cada osi a la atención primaria también

con recursos materiales y humanos necesarios la primaria es la verdadera primera línea en defensa de la salud

este país merece también porque es posible y porque es necesario que las listas de espera en los centros

a su ambulatorio por la saturación de la primaria

debe sentirse amparada y los y las trabajadoras son las que necesitan saber que ya van a llegar los refuerzos la educación es

de nuestra sociedad en la que toda la comunidad trabajadoras profesoras

están haciendo un esfuerzo enorme sin embargo no han estimado que sea oportuno ni reforzar la plantilla ni invertir más en infraestructura ni avanzar hacia la gratuidad de las haurreskolas tampoco aumentar las becas que en muchas familias supone la diferencia entre un horizonte de oportunidad y la desesperanza necesitamos abrir horizontes de futuro

por eso creemos que otro de los ejes sobre el que deben pivotar las políticas públicas en el futuro y sobre lo que llevamos insistiendo es en la creación directa

no a apelaciones al emprendimiento ni planes de formación para la colocación en puestos de trabajo que no existen empleo público y empleo digno de la mano un plan de empleo garantizado que nos permitiría apuntalar el maltrecho sector público vasco a la vez que daría oportunidades de empleo a quienes más lo necesitan esta voluntad se ha traducido también en una serie de enmiendas que

de empleo empezando digo por un plan de empleo garantizado para parados de larga duración con una dotación de veintidós coma cinco millónes

otro centrado en las agencias de desarrollo local de comarcas especialmente afectadas por el desempleo un plan de empleo orientado hacia los sectores emergentes en los que la administración pública puede hacer incidencia etcétera

nuestro sistema productivo y de movilidad también han consolidado como un voraz que consume recursos naturales muy por encima de las posibilidades de nuestro territorio y en este ámbito

un cambio de paradigma y sin embargo han insistido en mantener la extracción de combustibles fósiles en territorio vasco con las mismas excusas que hace treinta años

nuestro grupo ha presentado enmiendas para la liquidación definitiva de shesa y desde el gobierno se ofreció reducir a la mitad

pero finalmente se impone el inmovilismo y el continuismo de las políticas con los seis coma ocho millónes que nos costará

se podría iniciar el camino el camino hacía una empresa pública de energía para lo que por cierto nuestro grupo proponía destinar uno coma dos millónes o para invertir en generación de energía solar para autoconsumo en tejados de edificios públicos que pretendíamos hacer con tres coma siete millónes

sin embargo se sigue postergado la transición a las energías renovables

nos va a llevar la transición energética hemos apostado también por crear un plan de investigación desarrollo e innovación porque creemos que nos jugamos el futuro

en una buena posición de salida para el contexto postcrisis bukatzeko

llegamos hoy al último trámite para la aprobación de los presupuestos del gobierno vasco para el dos mil veintiuno

bultzada emateko tresna ekonomikoari argi berdea ematera etorri gara hona el grupo socialista tal y como dijimos en el debate de enmiendas a la totalidad venimos convencidos de dar nuestro apoyo a un proyecto presupuestario que establece una

y la utilización de todos los instrumentos que nos ofrece el autogobierno para trabajar en las nuevas transformaciones que son y van a ser necesarias para afrontar la salida de esta pandemia reforzados en nuestras estructuras económicas y cohesionados socialmente

del acuerdo de gobierno entre nacionalistas vascos y socialistas vascos garantizar la salud de la ciudadanía recuperar la economía y el empleo en euskadi

permiten encarar el año dos mil veintiuno y el inicio de esta legislatura presupuestaria y políticamente

generada por la pandemia y mirando a los retos del futuro

expansivos pero también unos presupuestos elaborados desde la responsabilidad y el rigor en la gestión presupuestaria por una parte representan la idea de concebir esta crisis también como un momento de oportunidad para abordar los retos de la transformación energética la transformación digital y la necesidad de reforzar nuestro estado de bienestar

y por otra parte ha quedado visible la apuesta por el valor de lo público tanto en su faceta emprendedora como en su faceta protectora y se cómo hemos establecido una estrategia de gasto público para salir lo antes posible de la crisis actual y hacerlo con pilares más robustos competitivos y con mayor cohesión social por eso estos presupuestos manifiestan el compromiso del despliegue de las políticas públicas

y mayor efecto multiplicador sobre el conjunto de la economía a corto y medio plazo contemplan un programa covid por un importe de quinientos cuarenta y dos millónes de euros

unas cuentas en las que ocho de cada diez euros se destina a gasto social donde el presupuesto de educación supone el veinticinco por ciento del total del presupuesto

euros por persona estamos ante un ejercicio presupuestario determinante y excepcional no solo

y medio plazo porque estamos sentando las bases presupuestarias

en cuanto al grupo vasco popular ciudadanos al igual que su enmienda a la totalidad las enmiendas parciales son muy similares a las presentadas en el presupuesto del dos mil veinte donde el grueso de las mismas se centra en el empleo el sistema de protección social

el apoyo a emprendedores y el sector público entre otros el empleo es la prioridad del gobierno vasco en estos presupuestos es el compromiso número uno

el reto es enorme y los socialistas vascos nos hemos comprometido primero con la generación de empleo de calidad

a las nuevas oportunidades que generará la transición económica en este sentido cabe destacar el proyecto nuevos perfiles profesionales y nuevas competencias para dar respuesta

es la que requiere mayor grado de innovación se van a explorar estos nuevos nichos de empleo para profesionalizar funciones

insertar nuevas tecnologías en el domicilio fomentar empleos de calidad y crear modelos empresariales colaborativos segundo con un servicio público más eficaz tenemos una tarea pendiente con el servicio público de empleo un nuevo modelo de intermediación

a las necesidades de las empresas y las personas en sus relaciones con el mercado de trabajo esta transformación va a suponer la mejora de todos los aspectos de actuación de lanbide desde las capacidades organizativas y la prestación de servicios hasta la digitalización

y a las herramientas de intermediación tercero con la elaboración de un proyecto que refuerce nuestro sistema de protección social el ingreso mínimo vital ha sido un gran hito pero se está enfrentando como ha reconocido el propio gobierno de españa a las dificultades de un crecimiento acelerado nosotros llegamos al modelo actual tras veinte años de experiencias pioneras

y sin duda va a ser un reto el ajuste entre ese sistema en crecimiento y este modelo vasco consolidado que aspira a proteger mejor pero mientras tanto

el derecho a la protección social con más de cuatrocientos cincuenta y nueve millónes de euros diez más que el pasado ejercicio en un presupuesto que en cualquier caso

de esa red de protección setenta y nueve millónes y medio corresponden a la prestación complementaria de vivienda que se mantiene porque se ha demostrado ser suficiente

el doble del crecimiento de los salarios de la administración pública y cuarto con el trabajo seguro osalan dispondrá de un siete coma dos por ciento más de presupuesto que el pasado año en cuanto al ámbito de educación el gobierno está realizando un gran esfuerzo en favor de la misma

que con un incremento del cinco coma siete por ciento respecto a dos mil veinte es

más alto con que nunca hemos contado además del programa covid están destinados noventa y cinco coma seis millónes de euros siendo el segundo destino más importante

si bien es cierto la pandemia del covid ha puesto de manifiesto la necesidad de reforzar y profundizar en la mejora de nuestro modelo educativo pero ustedes sitúan su gran prioridad educativa en la enseñanza concertada no la sitúan en el sistema educativo vasco y sí

que tiene como garantía la educación pública de calidad bien sea prestada directamente o a través de unos centros concertados que han conseguido

hace más de un año tras muchos meses de conflicto y negociación colectiva por lo que entendemos que no procede cuestionar el presupuesto en este ámbito ni introducir elementos de distorsión

tenemos en este parlamento en tramitación el proyecto de ley del sector público vasco en el que se incluye la creación de la comisión interinstitucional para la racionalización y dimensionamiento del sector público vasco en políticas sociales

se viene desplegando una acción continuada en materia de conciliación de la vida personal familiar y laboral

el doce coma sesenta y tres por ciento del presupuesto total del departamento muchas de sus enmiendas hacen mención al apoyo a los autónomos pequeñas empresas y emprendimiento

los apoyos al emprendimiento en economía social con casi tres millónes de euros o las vías directas de apoyo al emprendimiento por parte de lanbide con más de ocho millónes de euros y más de tres millónes de euros desde los presupuestos del departamento de turismo comercio y consumo así como el esfuerzo para seguir impulsando programas desde el departamento de industria

o bideratu que supone una inyección económica importantísima para las empresas vascas y especialmente para aquellas que son pequeñas y medianas empresas y por último ya que ustedes consideran que este presupuesto en el estado de gastos

quiero recordarles que en este proyecto de ley de presupuestos se articula un capítulo quinto con ocho artículos relativos expresamente a la gestión de los fondos next generation esta ley de presupuestos es la encargada de determinar

existiendo igualmente una identificación separada e inmediata para el seguimiento transparente de los fondos pudiendo crear por parte del departamento de economía y hacienda un programa multidepartamental que incorpore los nuevos créditos vinculados al plan de recuperación

en cuanto al grupo elkarrekin podemos izquierda unida quisiera en primer lugar valorar el proceso negociador y destacaría la actitud de su grupo

y sin líneas rojas y de ahí que resulte también relevante la oferta del gobierno vasco que suponía un impacto de noventa y siete millónes de euros para poder influir en políticas de salud

educación vivienda empleo medio ambiente y eficiencia energética a los socialistas nos parece que la oferta de negociación era generosa al suponer una capacidad de influencia del doce coma dos por ciento en el incremento de gasto real además de ser una oferta viable

una oferta realista y acorde con las disponibilidades presupuestarias existentes

dirigidas a políticas públicas y acciones concretas lo hemos intentado porque creemos verdaderamente que nos encontramos ante una situación tan excepcional que hubiera requerido altura de miras en la política y lograr apoyos más amplios en un momento complicado para la sociedad vasca ustedes han centrado muchas de sus enmiendas en los ámbitos de la vivienda los cuidados la calidad del empleo o la igualdad aunque es una pena que no hayan reservado tiempo para la defensa de sus enmiendas en este pleno aun con ello permítanme que al igual que lo hizo mi compañera susana corcuera en el debate de las enmiendas a la totalidad

las políticas de impulso al alquiler de viviendas con la ampliación del parque público de viviendas y las respuestas al derecho subjetivo de la vivienda ya adelantó el consejero iñaki arriola en su comparecencia presupuestaria la construcción de mil doscientos cincuenta viviendas protegidas en alquiler

destinándose el setenta y cinco por ciento del presupuesto de vivienda a gasto directo en políticas de alquiler

por su parte la cantidad para la prestación complementaria de vivienda entendemos que es una partida adecuada pero puede ser ampliable

ocho coma cinco millónes de euros en las prestaciones económicas de vivienda y prestaciones complementarias de vivienda hasta los doscientos setenta y cinco euros mensuales

del desarrollo reglamentario de la ley de vivienda con especial atención a la aprobación del decreto del derecho subjetivo de vivienda en el ámbito de los cuidados en breve vamos a aprobar la estrategia de cuidados en el entorno familiar

en el itinerario vital de las personas mayores esto exige

promoviendo un nuevo modelo de equilibrio con responsabilidad personal familiar colectiva e institucional que incorpore la perspectiva de género

se va a trabajar la modificación de la ley de igualdad y el gobierno vasco muestra su compromiso firme de seguir trabajando para avanzar hacia una sociedad

especialmente teniendo en cuenta la crisis generada por la covid y sus consecuencias la oferta del gobierno vasco a su grupo

fue precisamente la de la puesta en marcha de la estrategia de atención a personas cuidadoras no profesionales y el refuerzo de medidas para la atención a víctimas de violencia machista con lo que se podría haber impulsado aún más estos programas de haber llegado a acuerdo existe asimismo un compromiso contra el fraude laboral

y los presupuestos contemplan creación de nuevas plazas de inspección incrementar las campañas contra el fraude y los planes de igualdad

que este año se extienden a empresas de más de cien trabajadores y aquí en euskadi cuenta con un presupuesto específico para su divulgación junto a la campaña contra la brecha salarial estamos hablando de una consignación presupuestaria de un millón cuatrocientos setenta mil euros

la lucha contra la brecha salarial inspecciones que garanticen la igualdad o el fomento del emprendimiento y el talento femenino de los que el ochenta por ciento

aspectos todos ellos tratados y analizados en el marco del diálogo social y es precisamente en este mismo marco de la mesa de diálogo social donde se ha acordado a propuesta de la vicelehendakari idoia mendia la prórroga de los complementos de los erte

que se precisa para dicha prórroga no hay mejor forma de avanzar que la concertación y estas mesas y sus acuerdos están siendo un ejemplo para la política política que los socialistas echamos en falta en el debate presupuestario

estos presupuestos podrían haber sido mejorados o reforzados

en la negociación presupuestaria por parte de la oposición los socialistas esperábamos

entendiera que sumar fuerzas hacer política con mayúsculas en un momento y en unas circunstancias tan excepcionales como las que vivimos y tener altura de miras para acordar aportaría a la sociedad una mayor certidumbre ante el futuro

de las propuestas porque si bien los números dan para sacar estos presupuestos adelante abrir el acuerdo a otros grupos reforzaría y mejoraría los presupuestos

con la ley de cuerpos y escalas y ley de empleo público con la planificación de la mejora de la calidad del empleo público con las negociaciones en las mesas sectoriales de educación y salud

impulsando el despliegue del sistema vasco de servicios sociales aportando catorce millónes de euros al fondo de servicios sociales e impulsando la digitalización del sistema

estos presupuestos contemplan la atención a los sectores más afectados por las medidas sanitarias contra la covid y con un fondo especial para las contingencias que no puedan ser previstas por esa razón me detengo y hago un apunte que viene en las sumiendo del articulado de eh bildu

para crear un fondo para financiar las ayudas destinadas a sectores económicos que han visto limitada su actividad con una dotación a cargo de remanentes

esta enmienda podría ser calificada de totalidad dado que supone una variación positiva de las cantidades total de gasto y de ingreso pero más allá de valoraciones técnicas

con quinientos cuarenta y dos millónes de euros y una importante batería de medidas destinadas a los sectores económicos afectados por la pandemia y que podrán ser ampliadas

en función de las necesidades amaitzen ari naiz las enmiendas a la totalidad

no son una alternativa son complementarias a unas bases presupuestarias ya expuestas en sus aspectos más destacables no aportan cambios sustanciales

ni a los principales programas del gobierno tampoco vemos que en el departamento de turismo comercio y consumo

viable y realista para atender las necesidades de los sectores como la hostelería el turismo y el comercio finalizo

teniendo claro que cuando los socialistas votemos y rechacemos las enmiendas que han reservado para este pleno tanto el grupo vasco popular ciudadanos como eh bildu

va a contar con unos presupuestos que sostienen nuestros servicios públicos nuestro modelo de protección que sostienen los planes de empleo que atienden a los retos climáticos

y estas medidas urgentes para hoy y también las de mañana y las del futuro a corto y medio plazo constituyen el programa de gobierno

el programa para la reactivación económica y el empleo dos mil veinte dos mil veinticuatro son estos presupuestos del dos mil veintiuno son euskadi next y son los planes estratégicos que ustedes conocen

en la gobernabilidad de euskadi y del resto de instituciones y queremos ofrecer estabilidad la estabilidad y certidumbre que se necesita hoy más que nunca

y ya lo señalábamos en septiembre cuando se iba a conformar este gobierno lo repetíamos recientemente en el debate de las enmiendas a la totalidad y lo repetimos hoy nunca antes a tanta gente le es imposible prever su futuro

es más importante que nunca ofrecer respuestas firmes y claras desde las instituciones esa es con seguridad la misión más importante que tiene este gobierno

activar y utilizar los recursos colectivos para proteger a todas y cada una de las personas y los presupuestos son una herramienta para ello no son la suma de unos números mejor o peor hechos miden la iniciativa de un gobierno dentro de una realidad concreta

una herramienta que establece cómo responder al aquí y al ahora y que marca o no una dirección determinada para afrontar los retos que tenemos como país

afrontar los retos aplicando un nuevo enfoque a las políticas públicas desde las enseñanzas dejadas por esta pandemia pero también por la crisis anterior

y ahí está la diferencia entre este gobierno y lo que nosotros y nosotras defendemos la propuesta presupuestaria del gobierno y la propuesta

es muy sencillo y no es estrategia esto no es una cuestión de estrategia es una cuestión de modelos y la diatriba es muy sencilla o volvemos

o hacemos políticas para garantizar la sostenibilidad de la vida un modelo que permita construir proyectos de una vida digna de ser vivida para todos

planteamendu marxista iraultzailea no son cambios revolucionarios señor azpiazu

hori sei puntuko jaitsiera solo cuatro países europeos recaudan menos que la comunidad autónoma vasca con el impuesto sobre sociedades eta

faktura nola ordaindu nork ordaindu hitz egiteko garaia ez dela diozue que no toca claro que toca claro que toca

berak bere buruarekin bere norabidean bere interesekin fiscalidad no toca fondos europeos no procede y pasemos al tercer bloque de nuestro planteamiento

al proyecto presupuestario del dos mil veintiuno jaurlaritzak aurrekontu hauek aurkeztu zituenean adierazi genuen aurreikuspen oso positiboekin

okerra begibistakoa denez un presupuesto el que presentaron ustedes

pero los datos muestran que lamentablemente la crisis sanitaria y sus consecuencias se van alargar y por tanto

disponer de un presupuesto de una herramienta acorde con la realidad adibide bakar bat bi mila hogeiko aurrekontuetan

berdin berdina y esto es consecuencia del planteamiento errático que año tras año

no es un problema del marco presupuestario ni siquiera es un problema de viabilidad económica

errealitateari erantzuteko gabezi eta hutsune handiekin jaio ziren aurrekontuak el próximo lunes se cumplen dos meses el próximo lunes

y como decía ya el quince de diciembre de dos mil veinte estos no eran muy acordes a la realidad ni a las previsiones y a día de hoy once de febrero de dos mil veintiuno

y la previsible aprobación dentro de un rato en el parlamento vasco de estos presupuestos para el dos mil veintiuno pues aparte de haber pasado cincuenta y ocho días

a día de hoy tenemos más de setecientos doce personas ingresadas un sesenta y uno por ciento de personas más

a diez de febrero ciento sesenta y cinco personas ingresadas un cuarenta por ciento más

es decir un aumento preocupante en la presión hospitalaria además del cierre de quirófanos

y una atención primaria mermada hezkuntzan bildarratz jauna el quince de diciembre teníamos

a diez de febrero hace unos pocos días ciento ochenta y ocho aulas cerradas

a día de hoy en hostelería los municipios afectados por el cierre de la hostelería el catorce de diciembre había diez

hasta el día de ayer ochenta y uno municipios el setenta y cinco por ciento de la población en empleo erte del quince de diciembre al nueve de febrero doscientos ochenta y tres erte presentados mil doscientos treinta y tres trabajadores afectados desempleo en diciembre de dos mil veinte ciento veintinueve mil doscientos cuarenta personas

a enero de dos mil veintiuno renta de garantía ingresos diciembre de dos mil veinte cincuenta y seis mil doscientos diez perceptores en enero dos mil veintiuno

esta es la realidad estos son los datos transcurridos como decía cincuenta y ocho días mil trescientos noventa y dos horas

a día de hoy estos presupuestos están caducados eta

que si fuese necesario se activarían más recursos cómo que si fuese necesario qué tiene que pasar para considerar que es necesario activar más recursos

el problema sea que la percepción de lo necesario depende de preservar los intereses de los y las de siempre zer gehiago gertatu behar da ez al dago beharrik

pero yo añado además añado

coyuntura de la crisis climática del colapso de lo que

para nuestros hijos e hijas pero no hablamos tanto de dejar mejores hijos e hijas mejores personas para nuestro planeta y para ello lo que hace falta es fortalecer la educación

eta beraz horiek gutxienez badaude y el estado de tesorería general a treinta y uno de diciembre de dos mil veinte es de dos mil quinientos millónes por lo tanto creemos que el remanente

muy alto y creemos que son recursos que hay que activar porque hay una necesidad real en este momento

eta guretzat hori beharrezkoa da baina berriro bueno estamos en el si fuera necesario

en la viabilidad de las propuestas que hemos planteado sino en la realidad y en la necesidad de esas propuestas en este momento actual que el consejero de hacienda es dueño de su silencio pero es preso de sus palabras

una y otra vez ha estado repitiendo el si fuera necesario la representante del grupo socialista también lo ha hecho y los representantes del partido nacionalista vasco también

la diferente percepción de las necesidades aquí y ahora y por último y en cuanto a las enmiendas respecta y en cuanto al carácter de las mismas

la mayoría de las personas atendidas en residencias y las trabajadoras son mujeres la mayoría de trabajadores y trabajadoras de bajos salarios son mujeres la mayoría de afectadas por erte son mujeres la mayoría de personas que completan su pensión con la rgi son mujeres

son mujeres la mayoría de familias monomarentales que reciben la rgi son mujeres mundua

oposizioari erabaki espazioetan leku txikiena ere eskaintzeko este gobierno no ha estado dispuesto a cambiar nada de su proyecto presupuestario desde el inicio

un trámite más para la aprobación de unos presupuestos que han quedado como decía caducados unos presupuestos superados por la propia realidad unos presupuestos diseñados por un gobierno por un gobierno acomodado en su mayoría parlamentaria que es legítima y es una mayoría parlamentaria

pero es una mayoría que no les está asentando nada bien que no está sabiendo gestionar bien y esto

es en detrimento de la gente en detrimento de la gente de araba bizkaia y gipuzkoa

en un síntoma más que no se aprobaran ni se vaya a aprobar

es un síntoma más y esa incapacidad es un problema

un tanto autocomplaciente y a crítica hasta el punto de que este gobierno está superado por la realidad y como consecuencia ha elaborado un presupuesto como decía superado por

un nuevo estatus político que nos dote de más y mejores herramientas para poder decidir y dar respuesta a las necesidades de la gente

ha puesto más en evidencia aún esa necesidad pero esa necesidad era ya muy latente porque las cosas no iban también antes de la pandemia con un reparto cada vez más asimétrico de la riqueza que condena a amplios sectores sociales a una progresiva reducción de expectativas o dicho de otra manera a conformarse cada vez con menos

y en el que el gobierno de urkullu está instalado con una placidez preocupante eta

pero perderá la gente con unos presupuestos insuficientes en diciembre

aurrekontu batzordean se trata de unos presupuestos diseñados desde una posición acomodada por la mayoría y que un síntoma de ello es no aprobar ninguna enmienda a la oposición de las mil doscientos aproximadamente

que salvo el grupo vasco popular ciudadanos ningún grupo defendieron sección a sección en la comisión

sus propuestas en mayor o menor medida ya se contemplan en el presupuesto presentado tiene mérito de decir que nosotros no apoyamos sus enmiendas cuando ustedes ni siquiera hacen una exposición

ustedes sin argumento alguno más allá de contar con un programa político distinto

educación y políticas sociales eso sí yo insistiré y les daré unos ejemplos que ya hemos manifestado y que demuestran más allá de unas siglas

piden más planes de rescate para que no haya grandes olvidados para este gobierno no hay grandes olvidados

y en estos sectores tratamos de influir con el nuevo programa de apoyo financiero a pymes y a autónomos ejemplo de este gobierno desde el inicio de la primera ola de esta pandemia siempre ha estado acompañando y ayudando a las pymes y autónomos pero eso sí

con la que nosotros conectamos y a los que dedicaremos nuestros esfuerzos nuestro plan de gobierno

que incluirá un programa específico para pymes para reforzar los planes renove de maquinaria una apuesta clara por la industria cuatro punto cero con arraigo en euskadi

ciudadanos sobre la base de sus enmiendas parciales propone crear gastos por ejemplo

ayudas que buscan dar apoyo a la promoción en el mercado interno y luego es curioso eh que ustedes hablen de clientelismo tampoco está muy lejos de eh bildu de ello

donde se prevén actuaciones en municipios que son nominativamente identificados y que casualmente todos ellos están regidos por alcaldes de eh bildu gehiago

solicitan más gasto en salud cuando este presupuesto ya contempla un incremento de doscientos treinta y seis millónes dentro de la nada desdeñable cifra de cuatro mil ciento ochenta y tres millónes de euros para salud con casi setenta millónes de euros para inversiones en infraestructuras de osakidetza actuaciones en hospitales y osi centros de salud de atención primaria red de salud mental

remodelación de los bloques quirúrgicos y eso sí con un claro calendario de vacunación con los medios para ejecutar dicho plan porque sí

el principal problema que hay en torno a la vacunación es la falta de vacunas y la lentitud o el ritmo al que llegan las dosis a cada territorio osakidetza ha demostrado que tiene la capacidad y todos los recursos para hacer frente a una campaña

un cincuenta y tres por ciento más de lo habitual y la campaña concluyó con total normalidad

por ello desde marzo está en marcha un programa de apoyo emocional dirigido a ellos y a ellas

de incertidumbre y estrés no es esto poner las personas en el centro de nuestras políticas cuestionar nuestro compromiso con las personas y de ahí su voto desfavorable a este presupuesto

a las personas en un setenta y ocho por ciento y siempre ha sido así las cifras hablan por sí solas pero no solo son cifras euskadi tiene una sanidad pública y universal

y comparen pública y universal pero además de calidad

la atención de osakidetza se valora en un siete coma seis la claridad de la información en un cinco coma cinco siendo para un cuarenta por ciento por encima del siete la valoración del gobierno vasco en la gestión de la crisis en un cinco coma siete frente al suspenso de

sesenta y uno por ciento de la población considera que la fiabilidad de la información sobre las vacunas es fiable o muy fiable nada más que decir frente a la opinión de nuestros ciudadanos y ciudadanas

quien con un gran esfuerzo trabajan para mejorar nuestra salud y nuestro bienestar respeto y agradecimiento tercero empleo estos presupuestos cuentan con recursos para trabajar en pro del empleo de calidad incidiendo en el desempleo juvenil

destinando también recursos contra la brecha salarial para inspecciones que garanticen la igualdad el fomento del emprendimiento y el talento femenino siendo el ochenta por ciento la dotación para nuevos programas también refuerza los programas contra la violencia de género las subvenciones destinas a las asociaciones de mujeres se doblan se impulsan los programas de prevención de la violencia contra las mujeres hasta trescientos mil euros

de igualdad en empresas como ejemplos recientes el impulso entre eudel y emakunde de la primera guía a nivel estatal para orientar acciones en los municipios

en el entorno comunitario la perspectiva de género es algo transversal en este presupuesto

es curioso en este escenario de situar a las personas en el centro de las políticas y en particular a la mujer que elkarrekin podemos proponga suprimir el gasto del estatuto de la mujer agricultora y mujer rural

no es reseñable el reciente plan de prevención y gestión de residuos dos mil treinta anunciado por la señora tapia

siendo su objetivo reconvertir un ochenta y cinco por ciento de los residuos no peligrosos en recursos secundarios y reducir al menos el quince por ciento de los que van a vertederos con el objetivo de una reducción en un treinta por ciento de los residuos que se generen en euskadi en los próximos diez años y en esta línea

cuyos proyectos están orientados a la transición energético ecológica en un sesenta y tres por ciento que superan el treinta y siete por ciento marcado por europa

y prueba de ello el premio a nivel mundial del programa de compra y contratación pública verde del gobierno vasco que ha logrado enverdecer el cuarenta y seis por ciento de las compras de treinta y ocho organismos

de crear una partida para subvencionar los proyectos de autoconsumo energía solar

y con una dotación de seis millónes de euros puede que no haber reservado ninguna enmienda para este pleno sea indicador de la rectificación en ciertas materias

somos conscientes del reto al que nos enfrentamos y que debemos realizar un esfuerzo por ser más competitivos hori argi dago

una apuesta por la internacionalización veintitrés millónes para ello llevar la innovación hasta la última milla que llegue

de quinientos treinta y cinco millónes y todo ello teniendo muy presente el talento y como ejemplo de ello el pasado día dos que se aprobaban las bases del programa bikaintek

más de setenta personas con alta cualificación a través las cuales se mejorará la competitividad de las empresas en euskadi también cualificación de las mujeres véase como ejemplo

mujeres y más las ayudas a las familias señores del grupo vasco popular ciudadanos entre el departamento de igualdad justicia y políticas sociales y determinadas becas del departamento de educación a mí me suman ciento sesenta y cuatro millónes de euros pero es que además no deben

como entre otras la rgi y la prestación complementaria de vivienda que suman cuatrocientos sesenta millónes

a las prestaciones económicas vinculadas al derecho subjetivo a la vivienda cinco millónes y la consolidación y extensión de ayudas a la contratación para el cuidado de niños y niñas

que incluyen quince millónes más para ayudas de emergencia social seis coma seis millónes adicionales para subvenciones del fondo inor atzean utzi gabe ayudas estas

la pobreza energética y tras argumentar nuestra posición frente a sus enmiendas

no creen ustedes que son unos presupuestos para poder afrontar una situación complicada creen ustedes que no son valientes

no son acaso buenos estos presupuestos yo creo que estarán de acuerdo conmigo en que son unos presupuestos razonables para ayudar a afrontar esta crisis es por lo que no entiendo no cuestionan el fondo de

y solo plantean más gasto para aquello que ya el gobierno vasco tiene previsto

si fuera necesario aumentar ciertas partidas aumentar ayudas a sectores afectados por la pandemia a salud y a educación se hará pero no solo se hará

guk esan eta egin egiten dugu este presupuesto se ha confeccionado sobre la base de una estimación

actual pero eso no significa que sea inamovible en esa errónea presunción

más gasto más endeudamiento y más impuestos a los ricos motivo recurrente que tampoco nos sorprende cuando gobierno vasco destinaba el superávit a inversiones financieramente sostenibles o a amortizar deuda criticaban que el gobierno vasco aplicaba

aunque curioso es que su crítica no contemplaba la necesidad del cumplimiento de la ley de estabilidad que por cierto sigue en vigor estando elkarrekin podemos en el gobierno estatal o que los presupuestos presentados por eh bildu cumpliendo rigurosamente la ley de estabilidad en aquellos municipios o diputaciones forales gobernados por ellos no hubieran sido calificados como austeros en el pasado ahora

en la cual se acordaron nuevos límites de referencia de deuda y déficit y en el cual se reconoce a las diputaciones forales su capacidad de endeudamiento lo que da oxígeno también a los ayuntamientos

en aplicación de la política expansiva se endeuda hasta alcanzar los límites acordados en la comisión mixta ya no son los presupuestos austeros pero sí son continuistas por cierto

sí hemos llegado al límite rehagan sus cálculos ya que el presupuesto está elaborado agotando el objetivo de déficit y dos la ley de estabilidad no se deroga

ustedes saben mejor que nadie cómo funciona la ley y la ley de estabilidad repito sigue en vigor

lo que sí hacemos es afrontar la realidad como viene y establecer políticas económicas acordes a dicha coyuntura pero ustedes con independencia de la coyuntura siempre con el mismo lema más y más gasto siempre más cómo es la frase esta señor otero cuando la recaudación va bien mezcal y cuando la recaudación va mal también mezcal

eta baliabideak nahita nahi ez mugatuak es por ello que una definición clásica de la economía es la administración de recursos escasos así mientras los productos disponibles son finitos las necesidades son infinitas pero aquí parece no calar la definición clásica de economía es como si en nuestro programa electoral así se me ocurre dijéramos que para construir un país digno fuera necesario crear cuarenta mil puestos de trabajo en el sector público

eh bildu taldea eta beste alderdiak ere podemos taldea adibidez la cuestión no es cuánto sino cómo

cuántos puestos y dónde para ello este gobierno plantea primero la ley de cuerpos y escalas y luego las ope anunciadas

somos más de construir sobre bases sólidas y trabajar con rigor certezas y honestidad sin crear falsas expectativas

de conflictos a nivel mundial son ustedes quienes sin ningún argumento bueno sí con alguno pero falso o falseado

osakidetza para educación para la innovación y digitalización para las mujeres para el empleo

para la prestación complementaria de vivienda para los cuidados dicen ustedes no a todo ello a todo es curioso incluso al título de la ley bueno con una salvedad eh bildu que su gran aportación a estos presupuestos ha sido la de abstenerse a la votación al título de la ley

el gobierno ha negociado con ustedes para que partidos políticos con menor representación puedan plasmar sus propuestas en el proyecto presentado sin que ello implicase obviamente la ruptura de nuestro modelo y de un cambio de paradigma

elkarrekin podemos con quienes ha habido una negociación sincera sin simulacros

ha culminado sin éxito desde el partido nacionalista vasco queremos volver a agradecer al grupo elkarrekin podemos su predisposición a negociar

las propuestas ofrecidas por el gobierno vasco estamos seguros de que será un primer paso para conseguir apoyos en otras cuestiones dado que

ustedes quienes han admitido y agradecido el esfuerzo y la buena oferta realizada en la negociación presupuestaria

y en las reuniones de negociación es un buen camino a seguir y otros partidos de esta cámara deberían seguir su ejemplo

era positivo lanzar el mensaje de pactos más amplios una magnífica oportunidad para el acuerdo de dejar los vértigos políticos a un lado

con los grupos eh bildu y el grupo vasco popular ciudadanos quienes se han autoexcluido de la negociación en la primera reunión el grupo vasco popular ciudadanos fueron casi a registrar la enmienda a la totalidad eso sí en una cosa coincidimos

no puedo estar más de acuerdo hubo una falta de voluntad clara por parte del grupo vasco popular ciudadanos no quisieron negociar y presentaron directamente la enmienda a la totalidad no sé cuál es su relato pero estos son los hechos señor gordillo y si a eso le añadimos que a ustedes no les gusta ni e i te be ni el euskera

o emplear para justificar sus enmiendas el porcentaje de ejecución por ejemplo en educación

en educación eso es no conocer cómo funciona el departamento de educación si tal y como ustedes indican

que en años anteriores por tanto creo que deberíamos de trabajar con menos soberbia y más respeto lo mismo ocurre con eh bildu

gobierno vasco sin ninguna propuesta así es con las manos en los bolsillos y es al cabo de ciertos días cuando remiten por email su propuesta al gobierno vasco así es minutos antes de hacerla pública en una rueda de prensa

sin reunirse con el gobierno vasco van a dar cuenta de su propuesta en una rueda de prensa curioso es además que el texto de su propuesta sea prácticamente idéntica a la enmienda a la totalidad no sería que tenían redactada la enmienda a la totalidad y necesitaron unos días para darle forma de propuesta

comparen ustedes su actitud aquí en euskadi frente a su actitud en otros territorios bien cercanos presentan en euskadi una propuesta por valor de cuatrocientos veintinueve millónes de euros en aras a no llegar a un acuerdo documento que establece unas líneas rojas sobre la fiscalidad

por qué en euskadi no quieren negociar sin líneas rojas y en cambio sí lo hacen en navarra o en el estado

si exigen diálogo social y político al gobierno al menos ustedes en la confección de su documento deberían predicar con el ejemplo

garantía y flexibilidad informativa para que el aprovechamiento y maximización de los fondos europeos tenga un seguimiento y control parlamentario riguroso

así como la gestión relacional y económica con el estado unos fondos por cierto que fueron aprobados ayer en el parlamento europeo

ni siquiera su gobernanza pero euskadi sí cuenta con un programa propio

los recursos que lleguen se integren en nuestro presupuesto por cierto estarrona jauna no digan que solo se apoyó una resolución en el monográfico del dieciséis de junio

pero nosotros no siendo el grupo proponente nos acercamos a transar con ustedes y la respuesta fue no

en euskadi eh bildu exige cuatrocientos veintinueve millónes en su propuesta inamovibles y con líneas rojas

veinte coma cinco millónes entre comillas sin hablar de gobernanza en los fondos europeos y en navarra un apoyo por nueve coma cuatro millónes sin tampoco exigir compromisos políticos en temas fiscales se conforman con un mero estudio ni exigencias en el ámbito de los fondos europeos y aún menos sin exigir el marco político permanente de debate así exigido al gobierno vasco

y no requerírselos a gobiernos cuya existencia estabilidad y perdurabilidad dependen de uno mismo es de una lenidad política inexplicable a no ser que lo que se persiga con tal proceder sea otro tipo de réditos

porque ya lo han hecho en alguna ocasión que el grupo nacionalistas vascos y socialistas vascos cuentan con la mayoría absoluta en este parlamento el famoso rodillo sin embargo este argumento pierde su sentido si se repara a la legislatura anterior

y el tipo de oposición de eh bildu fue idéntica perdiendo oportunidades como la frustrante y frustrada negociación para los presupuestos del dos mil diecinueve considerando lo anterior estoy realmente expectante a conocer el motivo que ha llevado a la oposición a decir no

excusa para justificar su postura inmovilista podemos utilizará el incumplimiento del acuerdo dos mil veinte que les adelanto su nivel de cumplimiento se contestó en tiempo y forma según los plazos parlamentarios ni un día más tarde

o incumplimiento de los contenidos es un juicio de valor saben ustedes que está razonablemente cumplido pero además tienen una vara de medir bien distinta

en navarra siendo gobierno no pasa nada si no se cumplen escrupulosamente los acuerdos de dos mil veinte y así lo leo en el acuerdo de eh bildu para los presupuestos navarros del dos mil veintiuno dado que no fue posible la realización por parte del gobierno durante el año dos mil veinte

claro tanta comprensión tanta flexibilidad

es impensable en la comunidad autónoma vasca el grupo popular ciudadanos utilizará que no hemos cumplido el acuerdo sobre la reforma fiscal que ya le repito cumplido está

que les adelanto que el pormenor de gastos incluye un programa entero de covid y la memoria incluye justificaciones de pandemia y covid el presupuesto no solo es el texto articulado sino el conjunto de documentos que lo componen

que porque no se pone el nombre de un virus en el texto articulado estamos en presencia de un presupuesto continuista

será que no compartimos programa político que nuestros objetivos políticos son distintos

que hay muchos puntos coincidentes con lo que asumo que este tampoco será el motivo de su falta de voluntad para el acuerdo

para activar la inteligencia colectiva en este momento crucial será la falta de activación de inteligencia colectiva el motivo para el no a estos presupuestos en una cosa estoy de acuerdo

pero no en que la inteligencia colectiva no esté activada eh bildu la inteligencia colectiva se activó el pasado doce de julio y decidió y apostó por nuestro modelo si asumiesen y respetasen la decisión del pueblo creo que podría servirles para dejar a un lado los juegos políticos

sin excusas y críticas estériles la situación lo requiere aunque

en todo caso me gustaría estar equivocada y que tengamos al menos en un futuro cercano puntos de encuentro

el pasado viernes comentaba el señor otero y en relación con los fondos europeos que para ir a madrid deberíamos empezar siendo fuertes aquí

estaremos aquí pero para trabajar con humildad honestidad y sinceridad

cómo lo hacemos si mantienen una intensa disputa contra el gobierno vasco

creo que debemos ser serios si no llegamos a un mínimo acuerdo en euskadi cómo vamos a tener una única agenda

pero mientras tanto pues nos pondremos de acuerdo en algunas cuestiones algunas cosas pero a partir de ahí debemos empezar desde aquí el problema es que ustedes quieren ser la alternativa

enmiendas a estos presupuestos indicando que el pnv quería excluir a eh bildu de las negociaciones

no será que como eh bildu se considera la alternativa al pnv no está dispuesta a pactar nada con nosotros precisamente para proyectar que hay una alternativa y que son ustedes no será que eh bildu no le va a dar ni gota de agua al partido nacionalista vasco hasta que no logre desalojarle del gobierno

porque nosotros no estamos para estas guerras estamos para trabajar para reconstruir euskadi en estos momentos tan delicados para aunar fuerzas y trabajar duro en aras a lograr

en europa y en madrid pero veo que no todos tenemos los mismos objetivos

con cualquier desgracia o hecho reprobable demuestra el proyecto político de cada formación lo que no pueden hacer con un proyecto político lo quieren conseguir con la pandemia

la idea es ser un factor de orden en lugar de un factor de desorden construcción y diálogo frente a la confrontación unión y consenso frente a la destrucción errespetuz

buenos días de nuevo a todos no dedicaré demasiado tiempo en este turno

el último turno de este postureo democrático del gobierno para aprobar los presupuestos eso obvio que el juego

tenemos una idea clara y distinta de lo que son estas cuentas han decidido todo lo relacionado

en su dúplex del parlamento no han hecho ningún caso a las enmiendas y propuestas de los grupos las han mandado directamente a la papelera

han hecho uso de su mayoría absoluta una tiranía donde cuesta ver algo más que no sea que todo siga igual somos mayoría

este modo de hacer política llegará a su fin y a pesar del intento de silenciarnos de arrinconarnos

vox sigue creciendo ha venido para quedarse y el ninguneo que nos practican a este partido tercera fuerza política nacional a los vascos que nos han votado y a esta parlamentaria en particular irá en vuestra contra porque aunque hoy estoy sola en cuatro años tengo la certeza de que no lo estaré

producto de la mayor abstención jamás vista en unas elecciones ante la falta de legitimidad yo les invito sobre todo a tener humildad a no jugar

y que los grupos del gobierno no han perdido la oportunidad de darnos lecciones a toda la oposición

y por eso he escuchado con muchísimo interés lo que nos han contado los portavoces

yo la verdad es que después de escuchar con atención no he aprendido nada será un problema mío o será también un problema de la señora martínez grisaleña o será también un problema del señor hernández o será también un problema

será también un problema del señor estarrona porque yo creo que ellos ya lo dirán en su turno creo que tampoco han aprendido nada de las lecciones

nos han dado simplemente comienzo con las alusiones y luego me centraré un poco más en el presupuesto vamos a ver en el caso de la crítica que se hace

que las enmiendas que ha presentado nuestro grupo son muy parecidas muy parecidas a las que se presentaron al anterior presupuesto hombre claro si es que han presentado el mismo presupuesto otra vez pues claro que se parecen las enmiendas si es que

en un gran número de enmiendas que no obstante hemos presentado hasta ochocientos insisto ochocientos

evidentemente según su tesis esto es un problema de la oposición que es que no sabemos lo que es bueno para la sociedad

en este caso lo comparten un poquito con los socialistas sí que sabe lo que es bueno para euskadi yo señora berrojalbiz admiro el de verdad que le tengo mucho aprecio personal y

en defender en defender bueno lo que yo creo que a veces es indefendible no de verdad que admiro pues el trabajo que le dedica y yo creo que

pero vamos creo que estará bastante orgulloso lo que pasa es que ha empleado usted

pleno lo siguieran profesores de filosofía y de oratoria porque es que ha empleado usted

ojalá que algún profesor lo analice no es una pena que no pueda extenderme más en esto porque

básicamente su argumento es mire estos son los mejores presupuestos y el que no lo vea es porque no lo quiere ver bueno

es que ha conseguido lo que no ha conseguido nadie es que yo creo que la va a acabar fichando redondo para el equipo de sánchez para poner de acuerdo

y también me resulta curioso que se haya referido usted pues a las reuniones que se han mantenido con los grupos de la oposición

del señor en este caso azpiazu que no está desgraciadamente una pena yo creo que le habría encantado mi intervención pero claro es que que yo recuerde en la reunión no estuvo usted yo sí estuve

hablar con la información de la que yo directamente soy

está bien eso es el relato que ustedes han querido construir lo que pasa que hombre la realidad yo creo que todos la conocemos

al grupo nuestro de clientelismo ostras

pero vamos que llevan gobernando euskadi de manera directa o indirecta

hablar de clientelismo eso es para otro debate que me encantaría hacer

pide también respeto para osakidetza hombre yo creo que nosotros defendemos

osakidetza son todos los hombres y mujeres que la componen y que están luchando

y para garantizar la salud de todos los vascos y yo creo que la asunción de responsabilidad es algo que dejamos para otra comisión pero para recuperar el prestigio de osakidetza como dice mi compañera laura garrido

luego nos habla de la crítica de las partidas nuestras a familias no como ve estoy haciendo casi al revés porque como su grupo hace oposición a la oposición pues casi estoy yo ahora haciendo de gobierno no y entonces ahora tengo que defender mis propuestas de alternativas otra vez

a las familias teniendo en cuenta cómo está el tema de haurreskolak teniendo en cuenta que la escuela concertada en fin que le ahorra muchísimo dinero a la red pública etcétera pues hombre yo creo que ahí poco pueden decir pero bueno en fin son sus presupuestos nadie les niega legitimidad para presentar los presupuestos y eso es lo que hay y esos son los que se van a aprobar hoy aquí de eso no tenemos duda ningún grupo

vamos a hablar un poco de presupuesto como tal ingresos y gastos luego hablamos de gastos ya hemos hablado un poco pero de los ingresos claro el problema del presupuesto es que va a nacer obsoleto este presupuesto va a nacer obsoleto casi casi caducado

las previsiones económicas sobre las que se ha valorado lo que van a ser los ingresos del presupuesto

están obsoletas de acuerdo con las previsiones que están haciendo el resto de instituciones que trabajan con los indicadores que luego asume el gobierno vasco o sea para todo el mundo la economía va a ir peor en cambio en cambio

me parecían demasiado generosas luego lo confirmó la airef y luego lo están confirmando el resto de instituciones

yo creo que un presupuesto lo que tiene que partir es de una cosa que es la realidad todas las instituciones que usa el gobierno vasco para comparar previsiones las han actualizado menos el propio gobierno vasco le voy a hacer una pequeña numeración de sucesos el número de municipios con la hostelería cerrada era de cero el veinticinco de septiembre el treinta y uno de diciembre ocho es verdad que ahora mismo están abiertos pero hombre con el tema de la hostelería

el número de trabajadores en erte pues hombre se ha incrementado prácticamente un cuarto un veinticinco por ciento es que se han liquidado septiembre y enero quinientos tres empresas en euskadi quinientos tres empresas en euskadi que luego todo esto son también cotizantes

en fin el total de las ayudas a los sectores en crisis mire el total de las ayudas de los sectores en crisis ahí no ha habido variación ni las había antes

mire los indicadores que se utilizan para hacer un poco una previsión porque todo esto son previsiones

se utiliza mucho el gasto que se hace por ejemplo con tarjetas de crédito

tanto bizkaia como gipuzkoa están liderando en toda españa el diez por ciento de caída interanual claro con esta previsión con esta previsión y me voy a la página cuarenta y dos de los presupuestos que nos ha presentado el gobierno hombre se esperaba recaudar tres coma ocho

del doce coma cinco respecto a la recaudación de dos mil veinte hombre yo creo que

le insisto es que solamente en enero se han perdido doscientos cuarenta y siete empresas en euskadi por tanto la previsión de crecimiento del ocho coma nueve por ciento para el año que viene o sea para este año para el año dos mil veintiuno se queda más que obsoleta es que ya cualquier cualquier institución de las que utiliza habitualmente el propio gobierno

yo creo que lo que es a ingresos el presupuesto en mi opinión

está obsoleto en cuanto al tema de los gastos volvemos a lo de siempre la falta de ejecución

la falta de ejecución presupuestaria no es solamente un tema en educación evidentemente

que tuviéramos unos datos sobre ejecución presupuestaria un poquito antes

obtuviéramos solo hasta septiembre octubre con suerte al final del todo oiga es que yo creo que se podría tener un sistema

en todo caso todo este debate solo ha servido para ver o para comprobar una cosa y es y recupero las palabras de otra persona que admiro mucho

desasosiego decía aquel a la hora de enfrentarnos a este debate económico debate que considero fundamental pero del que no espero

cuando era portavoz de economía en el congreso de los diputados y concluyó con esto

un presupuesto aprobado sin consenso utilizando su mayoría absoluta se lo recriminaba entonces al partido popular el rodillo parlamentario

ni para los ciudadanos ni para nadie y la verdad es que el presupuesto que nos han presentado no es bueno ni para la economía ni para la ciudadanía ni para euskadi muchas gracias

eskerrik asko berriz mahaiburu andrea bueno pues la verdad es que solamente en la última intervención la señora berrojalbiz es la que

y voy a ir intentando responder a algunas de esas notas cronológicamente las he ido tomando me ha sorprendido la referencia

la apelación dramática que ha hecho pidiendo respeto y agradecimiento

claro ahora hace falta un poquito de valor para decir esto cuando quiero decir a quien le están haciendo las huelgas un día y otro y las manifestaciones no es a nosotras es al gobierno entonces respeto y agradecimiento creo que no es a nosotros a quien debería ir dirigida esa apelación

no yo creo que media hora de mi intervención la he pasado intentando explicar por qué consideramos

pues tampoco yo creo que también mi intervención de media hora prácticamente iba en esa línea

así que solamente con escuchar yo creo

que la respuesta a esta pregunta es clara hacía referencia a la ley de estabilidad con

del partido nacionalista vasco pero bueno la negociación hacía

de entendimiento sobre el proceso de negociación no no existe ninguna disparidad yo sí que querría decir y es verdad que en aquel momento del esfuerzo por la negociación y sigo manteniéndolo sí hubo un esfuerzo sincero de negociación pero sí tengo que decir otra cosa y es que esa negociación

este pleno y sin embargo se decidió cerrar el plazo de negociación a los cuatro días en este fin de semana eso fue entre otras cosas eso es lo que le hace inviable impracticable y lo que le dota

en cuatro días no se puede negociar un presupuesto y otra cuestión

parece ser que para la oposición en general cuanto peor mejor y yo

qué manía de plantearlo así de entender la contraposición de ideas

como un ataque además a lo que parece que es la infalibilidad del gobierno a la hora de evaluar los retos y

a todos hemos planteado doscientos veintitrés enmiendas parciales y se nos ha dicho que no a todas hemos dicho que se reexamine y se reelabore el presupuesto

que no hemos considerado que este es un presupuesto que el mismo que el del dos mil veinte con un pequeño parche que es el de la emergencia covid y nos parece pues que efectivamente esto no es suficiente y

la verdad es que tengo que decirle también que terminamos este proceso pues muy preocupados como yo creo que por otra parte también queda el resto

eskerrik asko presidente andrea el objetivo del gobierno es garantizar la salud la reactivación económica y el empleo

se han utilizado todas las herramientas económicas y financieras para presentar unos presupuestos extraordinarios para un momento y coyuntura excepcionales no son iguales

no son continuistas sus enmiendas sí lo son el mayor gasto público nunca antes planteado

pero el rigor y la responsabilidad en la gestión de las cuentas públicas ha sido siempre una impronta de los socialistas vascos que también hemos querido dejar patente en estos

aprovechamos señor hernández la capacidad económica que nos da el concierto económico sí pero la gestión presupuestaria y financiera también debe ser prudente y rigurosa y lo principal es que no se han presentado enmiendas parciales

no ha habido ningún paquete de enmiendas que indicara un nuevo modelo de gestión pública en ningún ámbito los términos refuerzo impulso acompañamiento ayudas ha sido la tónica de las enmiendas planteadas por lo que sinceramente tampoco se entiende las enmiendas a la totalidad no se puede obviar que se parte de una mayoría absoluta porque los socialistas vascos nos hemos implicado en la estabilidad institucional

y esa estabilidad institucional no ha sido un problema como a veces se justifica la oposición al contrario intentamos aunar esfuerzos

y difícil por eso la voluntad de negociación y acuerdo ha sido sincera y proactiva pero es curioso que los grupos vox y grupo vasco popular ciudadanos que han sido los que más han apelado al proceso negociador son los que se han autoexcluido efectivamente desde el principio

las enmiendas parciales no han contado con el apoyo de los socialistas vascos porque no aportan insisto cambios sustanciales ni a las medidas del programa covid

ni a los programas de los departamentos de trabajo y empleo

donde ya están incorporadas muchas de las partidas que los grupos plantean como novedades y tampoco vemos y vuelvo a insistir en esto que el departamento de turismo

viable y realista para atender a las necesidades de los sectores que tan mal lo están pasando como son la hostelería el turismo y el comercio en su conjunto las líneas de financiación y medidas establecidas para pymes y autónomos

las ayudas directas las ayudas extraordinarias por importe de setenta millónes en dos mil veinte

son algo más que cifras que si sumamos suponen más de doscientos millónes y que son certezas para quienes peor lo están pasando en algunos subsectores

son complementarias a unas bases presupuestarias sólidas y por eso nos parece que la oposición no ha priorizado las soluciones a las necesidades y retos de hoy y del futuro del principal grupo de la oposición no solo

para la crítica sino también su mejor versión para las propuestas la ciudadanía espera soluciones por ello hoy vamos a aprobar partidas y programas para gestionar lo urgente y para sentar las bases de un futuro de cambio en euskadi mila esker

con respecto por ejemplo a la prestación complementaria de vivienda la cual dice usted que ya es suficiente en la actualidad pero hay que recordar que lleva diez años congelada

somos conscientes que ustedes tienen una especie de contrato de permanencia con el pnv y que su margen también es limitado pero por el hecho de que realmente

porque diez años de congelación de dicha ayuda de esa cuantía cuando además había mostrado disposición

aumentarla a través de las enmiendas que había hecho un grupo parlamentario y resulta que como no hay acuerdo no se hace es algo que realmente nos preocupa pero bueno

esa actitud de autocrítica y de reconocimiento de que estos presupuestos como en política como en la vida misma siempre hay margen de mejora

señor gordillo a mí también me gusta aprender y me gusta aprender sobre todo cosas nuevas y es algo que me apasiona y no le puedo dar la razón porque hoy en este pleno

por un lado que en camboya no hay sanidad pública y que el pnv y este gobierno se conforman con el aprobado esas dos cosas he aprendido hoy en base a los datos

del gabinete de prospección sociológica y además señora berrojalbiz que usted

como euskal herria bildu a que este gobierno en los plenos de control nos haga oposición a nosotros

este último trámite presupuestario en que los grupos que sustentan al gobierno o el principal grupo el pnv

y creo que es la única en la que estamos de acuerdo estamos de acuerdo y a la que usted muchas veces hace alusiones pero ahí estriba la diferencia nosotras y nosotros no hacemos

y el sistema electoral que tenemos dotado en este país les ha dado como consecuencia una aritmética parlamentaria que les supone estar en mayoría absoluta y conformar un gobierno la inteligencia colectiva habló por eso la redición de este gobierno perdió cincuenta y dos mil votos por el camino y el proyecto que presentó eh bildu a la ciudadanía

anticiparse su resistencia a realizar gastos que son inevitables

y acuciantes su forma de entender el diálogo social y político la forma de actuar que tienen algunos de sus cargos como está quedando en evidencia su autocracia es el propio desarrollo de los acontecimientos el que les está situando ante la crítica de opinión pública arazoa ez gara gu

está claro que están teniendo ustedes el gobierno están teniendo malas semanas políticas

en la gestión de esta pandemia ha quedado claro y está quedando claro

que eran obsoletos en enero y que han quedado caducados

y hoy hay mucho que hablar y de eso hemos estado hablando al respecto y eso es lo que hemos venido a hacer pero si ustedes quieren chapotear en el barro chapoteen ustedes solos pero por favor no salpiquen

activar y utilizar los recursos colectivos para proteger a todas y cada una de las personas y que no dejemos a nadie atrás y no un gobierno que niega la propia realidad instalado en el wishful thinking

con cero margen de mejora asumiendo que hay cero margen de mejora y que ha traído como consecuencia además un presupuesto no apegado a la realidad diseñado para la recta final de la pandemia como decía en el primer turno de palabra no

nos podemos permitir un gobierno superado por la propia realidad y las expectativas y por eso y por no alargar tampoco más la sesión de hoy gaurko hitzartea

baina gobernu honetatik haratago pero más allá de este gobierno y a pesar de este gobierno a pesar de él aquí hay una gente aquí hay un país que no es la primera vez cae pero que siempre siempre

de forma colectiva y esta vez así va a ser también porque nos queda mucho por hacer nos queda mucho por construir porque las mejores páginas de la historia de este país están aún por escribir beraz

eskerrik asko legebiltzarburu andrea nietzsche yo llamo mentira a no querer ver algo que se ve

enkaje ezin hobea hoy ha quedado sobradamente demostrado que son unos presupuestos valientes y también muy sociales gracias entre otras cuestiones y planes a estos presupuestos

tasa de pobreza si bien debemos seguir avanzando autokritika egiten dugu más aún

tal y como lo hemos plasmado en nuestros objetivos de país situando a euskadi entre los cinco países europeos con menos desigualdad para alcanzar estas tasas la rgi tiene un papel fundamental

un aumento progresivo y constante históricamente no comprendo la crítica de elkarrekin podemos cuando la pensión no contributiva en españa ha aumentado el mismo porcentaje y no han hecho nada para remediarlo ustedes también han defendido en las cortes generales que lo importante del ingreso mínimo vital

luego es curioso que en esta ocasión y aquí su valor protector quede cuestionado idéntica cuestión con las pensiones dignas y su vinculación al salario mínimo y hasta los polémicos mil ochenta euros

realizar un estudio sobre la situación real de las pensiones reconociendo que la normativa

un estudio pero claro estas vaguedades e hipótesis en navarra se reconvierten aquí por parte de elkarrekin podemos izquierda unida y eh bildu en imperativo

política que manteníamos en mil novecientos ochenta y nueve y seguimos manteniendo políticas coherentes los objetivos siempre ha sido el mismo aquí en madrid y en europa no cambiamos en esta crisis nuestro objetivo ha sido mantener abierto el país

izatea una apuesta más global porque lo que quiere la hostelería el comercio las agencias de viajes es trabajar y lo que quieren los jóvenes es ir a clase a estudiar presencialmente

y cuando no ha sido posible hemos apoyado y lo seguiremos haciendo a los sectores más afectados

ciento cuarenta millónes para actuaciones extraordinarias que contemplarán nuevas actuaciones para los sectores más castigados un programa de estímulos a diversos sectores por valor de quince millónes de euros en el departamento de consumo comercio y turismo

se dieron a conocer nuevas medidas de apoyo dirigidas al sector turístico veintiuno millónes pioneros incluyendo las agencias de viajes el plan de reactivación del pequeño comercio dotado de siete millónes

pero además el consejero ya ha anunciado que están trabajando en un plan para los sectores más afectados del comercio y un nuevo programa de ayudas a la hostelería vasca

en este presupuesto que implican políticas estructurales que van más allá en algunos casos incluso de nuestras competencias

que nos plantean limitaciones a los precios a la energía modificaciones en materia de empleo y su reconversión el ingreso mínimo vital

en muchas de las políticas que ha citado por ejemplo en combatir la pobreza energética nosotros les acompañaremos en el camino y complementaremos las ayudas

no tenga ninguna duda sin perjuicio de que ustedes sean gobierno allí y nosotros oposición

y trabajar quienes formamos parte del partido nacionalista vasco somos conscientes de que nuestras decisiones deben encaminarse a conseguir lo que mejor resulte para este país y sus gentes siempre fue así

buscando siempre el bienestar colectivo el mejor porvenir para euskadi pues es el objetivo que nos guía con inteligencia con perspectiva y también con transparencia

orgullo de formar parte de la vanguardia de un movimiento humano con ciento veinticinco años de vida que ha demostrado en todo tiempo en los buenos y en los malos momentos dignidad humanidad

no creo que otros partidos políticos puedan sentirse tan orgullosa de la historia de su partido como lo puedo estar yo del partido nacionalista vasco o quizá sí en función del relato el movimiento se demuestra andando y los hechos son los que

el contexto ha cambiado pero nuestra centralidad no nosotros acordamos con el partido popular o con elkarrekin podemos izquierda unida pero no cambiamos nuestra forma de actuar beraz nahi izan duenak

para poder influir en políticas de salud cuidados igualdad y violencia de género educación prestación complementaria de vivienda

incluyendo para ello propuestas en ámbitos como la vivienda en la que el gobierno vasco les proponía poner en marcha un sistema de control de precios de alquiler que por cierto sí que han aceptado cara a los presupuestos del ayuntamiento de vitoria pero que aquí les parece insuficiente o en materia fiscalidad donde ustedes como gobierno en navarra han ofrecido a eh bildu este planteamiento para la reforma fiscal

dicen ustedes que el mismo compromiso que les ofrece el gobierno vasco tiene un valor ínfimo y en el ámbito energético ofreciéndole por ejemplo el compromiso de no realizar nuevas solicitudes para exploraciones cuando uno quiere pactar no se asusta cuando le ofrecen una oferta que avanza en aspectos que uno está reclamando hasta el punto de no querer analizarla

que la decisión del no era previa a la negociación nosotros hemos tenido una predisposición sincera y honesta con propuestas claras en línea con su modelo político que a buen seguro con altura de miras hubiesen sido sobradamente aceptados un presupuesto que todas y todos podrían reconocer

es muy razonable social y económicamente y que con clara voluntad política podría haber sido apoyado por la gran mayoría de esta cámara

no es hacer oposición a la oposición es defender nuestro trabajo

y que no estuviera en las negociaciones no implica que no sea consciente de las actitudes de cada partido político porque

ibais a los medios de comunicación a contar vuestra

es como ver que cómo va en la autopista en dirección contraria y cree que todos los demás están locos pues esto es igual que no apoyen los presupuestos toda la oposición

la principal es que la política es el arte de lo posible y en segundo lugar es que tienes que aceptar tu posición relativa

implica descalificar a la ciudadanía vasca que ha depositado su confianza en nosotros

porque cuando se pierde corremos el riesgo de dar pasos a derivas totalitarias y peligrosas

útil con voluntad de suma propicia de un modelo de negociación presupuestaria realista

una negociación presupuestaria al uso aunque quizá lo que hace dos días para la izquierda abertzale era esto era venderse por un plato de lentejas sin embargo

una posición disolvente que nunca suma el resultado en un debate presupuestario

desde el maximalismo con reclamaciones desmedidas a dónde nos lleva el rechazo sistemático a todas las propuestas también a las presupuestarias de las instituciones vascas

nos propone deben dejar de poner palos en las ruedas constantemente el cuanto peor mejor

nosotros siempre hemos trabajado trabajamos y trabajaremos por el bien de euskadi lo que más les duele es que los grupos que sustentan al gobierno que el gobierno vasco tiene ideas para avanzar

este presupuesto y actualmente con un claro objetivo y así lo dijo el lehendakari salud personal y salud económica este es el bien común compartido

y lleve varios meses lanzando proclamas en aras a ir forjando un discurso contrario no está diciendo la verdad

quiero agradecer a todos y todas los consejeros y consejeras y a todo su equipo al señor azpiazu por sus ideas innovadoras la apuesta por la investigación y el desarrollo por más digitalización

yendo hasta la última milla por su labor y esfuerzo por la confección en un momento tan complicado de este presupuesto que apuesta por las personas por su salud por su protección social por su educación

treinta y cuatro contra beraz onartuta geratu dira eta horrenbestez